lehendakari y personas que han venido a escuchar el debate sobre esta cuestión sobre la que hemos debatido bastante en los últimos años en este parlamento el asunto del fracking voy a explicar brevemente cuál es nuestra posición

a esta cuestión nosotros como reiteradamente hemos señalado en los debates que se han planteado en esta cámara

no defendemos la prohibición total del fracking hemos repetido siempre los mismos argumentos que no sé si son más o menos populares

en fin todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes y obviamente también el fracking como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales de lo que se trataría

tal y como propuso el parlamento europeo que el fracking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo elevado se trata por lo tanto de que la regulación legal sea exigente para reducir el riesgo tanto como sea posible ya sabemos que ninguna fuente de energía o técnica de extracción

se trata por lo tanto de reducir ese riesgo al mínimo pero rechazamos en todo caso la prohibición total por ello presentamos el

la regulación del fracking y en aquella iniciativa señalábamos algunas cosas como las siguientes el coste de la energía es uno de los factores fundamentales de la competitividad económica con repercusiones directas sobre la economía del país y del empleo es decir sobre el bienestar del conjunto de la sociedad en última instancia

por lo tanto la exploración investigación y valoración realista de nuestros recursos en hidrocarburos y la viabilidad técnica económica y medioambiental de su explotación tanto de los recursos convencionales como de los no convencionales tales como el gas obtenido mediante fracking o la extracción de metano en capas de carbón

hidráulica masiva pueden producir daños medioambientales severos

preventivas sin embargo en nuestra opinión la solución no es prohibir el fracking ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias sino establecer criterios legales rigurosos para autorizar la exploración

con un daño medioambiental mínimo y reparable no existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables por lo que la misión de la política energética y la misión de todo representante

en términos de eficiencia coste impacto medioambiental y sostenibilidad regulando y evaluando constantemente las condiciones y requisitos

exploración y en su caso explotación del recurso es absolutamente necesario conocer los posibles recursos energéticos del subsuelo y en ningún caso

en nuestra opinión la investigación y la exploración siguiendo estos principios upyd presentó y mantiene una serie de enmiendas parciales

once una serie de enmiendas que registramos en este parlamento para defender todos estos principios y asegurar que la exploración investigación y explotación

se llevaran a cabo con todas las garantías medioambientales en todo caso en fin estos principios estas ideas no han sido finalmente

en el texto legal que hoy se vota tampoco ha habido margen para negociar con el resto de grupos y lo cierto es que eh bildu el grupo socialista y el grupo popular han acordado vetar definitivamente el fracking en euskadi

a la abstención en todo caso nosotros seguiremos dispuestos como siempre creo que lo hemos estado a seguir debatiendo con el resto de grupos tantas veces como sea necesario y evidentemente también a escuchar a la ciudadanía qué es exactamente lo que piensa sobre esta cuestión a informar a la ciudadanía y a escuchar a la ciudadanía eso sí nosotros nos hemos comprometido y nos seguimos comprometiendo a debatir sobre esta cuestión de manera realista de manera rigurosa y de manera lo más científica posible y alejándonos

populistas o electoralistas que pueden dar votos pero no solucionan

estas son nuestras ideas ahí están nuestras enmiendas no saldrán adelante pero en todo caso ahí se recogen

ha sido muy paradójico muy paradójico ver como miles de ciudadanos y ciudadanas han tenido que robarle su tiempo a su trabajo a sus amigos a su ocio para poder parar el fracking y mientras tanto

destinando el dinero de esos ciudadanos y ciudadanas a impulsar el fracking el despotismo ilustrado del fracking todo para el pueblo pero sin el pueblo

dugu hoy tenemos la oportunidad de aprobar la mejor ley que proteja a nuestra ciudadanía vasca

no lo vamos a conseguir por eso nos vamos a abstener hoy hemos votado dos modelos de ley y vamos a votar dos modelos para dar contestación a esta pregunta

o el modelo b con las mismas tres enmiendas adicionales más una moratoria de cinco años solamente se puede aprobar un modelo de ley y hay dos opciones

adicional de cinco años el partido nacionalista vasco cree que la ley que mejor protege a la ciudadanía vasca es la aprobada hoy y es la que se va a aprobar hoy más la moratoria nuestra de cinco años con estos tres años de posible prórroga y con la creación de una creación científica en colaboración con la administración del estado

es la que creemos que mejor protege a la ciudadanía vasca esaten digute luzamenduak ziurgabetasun juridiko handiagoa sortzen duela estatuarekin

legea onartuta egon edo ez se nos dice que una moratoria genera más incertidumbre jurídica con el estado a la ley aprobada hoy

inconstitucionalidad en su intento de moratoria por dos años lo que no nos dicen es que andalucía jamás desarrolló y aprobó su ley de moratoria

segundo que nuestra moratoria es una moratoria en colaboración con el estado con una comisión científica integrada por ambas administraciones gobierno vasco y estado

la ley aprobada no por lo tanto seguimos creyendo que nuestra moratoria habría completado a esta ley que vamos a aprobar hoy para así entre todos proteger mejor a la ciudadanía vasca pero sí es cierto que tiene una virtualidad este período de tiempo para aprobar esta ley y es que hay grupos que ya no solo cumplen en las leyes del estado sino que también se preocupan de no incumplirlas creo que esta imagen de protección

es buena para que la ciudadanía vasca visualice esta protección de determinados grupos políticos aun así creemos que desde el partido nacionalista vasco

algo más y por ahondar un poco más

en estos cuatro años hoy vamos a cerrar una etapa que comenzó oficialmente allí por octubre del dos mil once entonces desde aquí en primer lugar

por todo su compromiso durante estos cuatro largos años creo que han hecho un trabajo que han sido capaz de movilizar a toda la sociedad

en situación de riesgo estaba entonces en ese aspecto todo ese trabajo desinteresado ahí está

justamente la semana pasada incluso con la propia plataforma y los partidos por intentar conseguir el máximo consenso

por intentar plasmar también ese principio que teníamos al comienzo de la ponencia de los partidos que habíamos presentado enmiendas entre lo que era el partido socialista eh bildu y el partido nacionalista vasco de no llegar hoy a este pleno

un consenso ese consenso ya está entonces por esa parte nuestra felicitación pero sí que creemos que nuestra moratoria habría complementado mucho mejor a esta ley no se trata de de lo qué es la incertidumbre jurídica sí que hemos intentado poner un poco de rigor a este asunto sí que se nos ha criticado también en abundancia este hecho pero la realidad es que hasta en mayo de este mes todavía recibíamos informes del estado

es decir que cuando en enero queríamos correr y aprobar esta ley lo importante es que durante estos últimos años o esta ley con estas inconstitucionalidades que ha habido sí que ha demostrado que tanto la plataforma como todos los grupos políticos

de esa manera no se podía aprobar en este parlamento en ese aspecto ha sido positivo que hemos

todos los grupos de intentar buscar una solución y sabemos que no es una solución fácil

en la lista de comparecencias pues al final debido a la gran carga política que ha cogido este tema

pese a que algunos eran profesores de universidad y habían escrito varios artículos sobre este tema del fracking es cierto que hoy es ya la última oportunidad de este primera etapa que vamos a cerrar hoy

también es cierto como comentábamos la semana pasada que no podemos preguntar no es porque no podamos sino porque no hay tiempo material y no tenemos esa costumbre de

que han presentado una ley de prohibición total qué modelos de los dos modelos le gustaría que aprobásemos hoy en el parlamento

como eso no es posible preguntamos también a la plataforma y la plataforma también lógicamente con todo el bueno trabajo que está haciendo tampoco tiene

en manos de los partidos políticos que hoy representamos este parlamento vasco lo que es aprobar esta ley en ese aspecto yo creo que es un paso más

pero sí que es cierto que nosotros creíamos que podía complementarse mejor con estas enmiendas eskerrik asko eskerrik asko carro

sí gracias presidenta se decía desde el grupo de eh bildu que esta ha sido una historia de lucha y es cierto ha habido miles de ciudadanos vascos que en los últimos tiempos
han tratado de defender sus ideas y recogieron firmas en un momento determinado para en euskadi la prohibición del fracking y nosotros obviamente esto lo reconocemos pero evidentemente lo que no defendemos es que en euskadi haya

y efectivamente por parte del grupo eh bildu se nos pida que aprobemos esta ley de manera unánime

luego se va a debatir también sobre la ley de custodia compartida

miles de firmas también y creo que sería injusto pedir también en ese caso

que votaran a favor de una ley que no comparten y por lo tanto nosotros no podemos votar a favor de una ley que no compartimos reconocemos el trabajo realizado por las plataformas

han defendido sus ideas con convencimiento con rigor con seriedad y que las han tratado de defender en este parlamento igualmente

del grupo socialista defendió el fracking en un momento determinado pero consecuencia posiblemente de algún tipo de reflexión interna defiende después

nosotros esto también lo respetamos no tenemos ningún problema respetamos todos los debates de este parlamento siempre que sean debates serios debates rigurosos

como este por lo tanto yo quiero agradecer sinceramente a todos los grupos políticos y a todos los ciudadanos vascos que durante los últimos años han defendido de manera coherente sus ideas y han defendido también una posición determinada en relación a esta cuestión nosotros también de hacerlo no vamos a apoyar la ley porque no la compartimos pero evidentemente cuando estos debates que se han producido se han llevado a cabo

en debates enriquecedores ciertamente no ha sido siempre así muchas veces se han utilizado argumentos populistas o demagogos en fin en todo caso nos quedamos con esos debates que sí que han sido enriquecedores y nosotros lo reconocemos creo que la política en general necesita objetividad y necesita seriedad y eso es lo que hemos tratado de hacer

ningún tipo de problema en quedarnos solos y creo que la consejera aquí presente hoy del gobierno vasco creo que en fin va a estar públicamente acompañada por este grupo en parte no porque

podemos decir que su intervención ha sido bastante dudosa o dubitativa pero en todo caso también lo respetamos

no tenemos ningún problema y en el futuro cuando tratemos de esta cuestión actuaremos siempre de la misma forma estemos en minoría o estemos en mayoría

las votaciones por lo tanto enhorabuena a todos los ciudadanos y a todos los grupos políticos que durante todo este tiempo han querido traer a esta cámara un debate serio y riguroso

me extraña que las representantes del grupo socialista y el grupo popular no hayan querido intervenir en este debate y defender su ley pero en todo caso entiendo que

en la explicación de voto aunque creo que lo más razonable hubiera sido que ustedes hubieran intervenido en el debate ya digo para defender la ley que va a salir aprobada
con su apoyo gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta señorías el grupo popular vota a favor de la proposición de ley de medidas

porque con el trabajo de ponencia lo que hemos hecho es adaptar el articulado de la ley al título cosa que no venía en el original objeto

sí tenemos competencias el texto original del articulado de la iniciativa legislativa prohibía expresamente el fracking los tribunales ya se han pronunciado sobre estas prohibiciones en otras comunidades autónomas

rechazado el falso dilema el perverso dilema fracking no fracking sí el grupo popular desde el primer debate que se suscitó en esta cámara

exploración de hidrocarburos no convencional hemos mostrado la preocupación sobre cómo se regulaba esta actividad cómo se gestionaban los residuos

siempre hemos apostado por explorar y explotar en caso los recursos energéticos

de cualquier manera no todas las zonas pueden acoger esta actividad y entendemos desde el grupo popular que es necesario proteger aquellas zonas más sensibles un ejemplo es el acuífero de subijana reserva de agua de álava y de nuestros vecinos vizcaínos porque no sé si saben pero en el país vasco la zona seca abastece de agua a la zona húmeda acuífero

humedales naturales y en general numerosos hábitat y especies catalogados a nivel europeo

desde el grupo popular entendemos que debemos centrar nuestra atención en regular esta actividad y en la medida que se establezcan los estándares de regulación

será más o menos segura estados unidos

elevado las exigencias medioambientales especialmente en dos aspectos uno

y otro referente a la recuperación y tratamiento de fluidos entendemos desde el grupo popular que los artículos tres y cinco de esta ley en definitiva lo que solicitan son informes técnicos de especialistas sobre las características geológicas

socio económicas sobre las zonas donde se va a realizar la actividad de fracking y los efectos que se derivan de la misma además de los informes pertinentes sobre riesgo de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos será el resultado de los informes quien determine

si se autoriza la actividad o no y las medidas correctoras que se deben aplicar

cuatro dice que la estrategia energética vasca deberá contar con evaluación medioambiental estratégica tal y como exige la ley de evaluación ambiental del gobierno central

la obligatoriedad de someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos que requieran la actualización de técnicas de facturación hidráulica esta ley

deben contar con evaluación ambiental estratégica hemos botado en contra de las enmiendas

se limita a una moratoria para esta ley no entendemos desde el grupo popular como el partido nacionalista vasco

no entendemos sabemos además que la moratoria va a ser recurrida por lo tanto qué establece qué mejoría qué modelo

de ley qué modelo plantea el grupo nacionalistas vascos el grupo del gobierno es

carece de seguridad jurídica ya se han pronunciado los tribunales sobre ello por lo tanto es difícilmente entendible

el ocultismo el no dar información estos proyectos son del año dos mil seis y anterior por lo tanto

gracias presidenta buenos días a todos en primer lugar decir que el grupo parlamentario socalista interviene en la explicación de voto en cumplimiento del acuerdo desde el principio quien participa en las reuniones sabe por qué se interviene en explicación de voto o en el turno a favor o en contra

en torno al fracking un tema que hemos debatido en múltiples ocasiones y un tema en el que desde luego el grupo socialista ha mantenido su posición porque en contra de lo que algunos

el grupo parlamentario socialista nunca dijo sí al fracking y si no miremos las hemerotecas

la iniciativa legislativa popular por eso creo que es justo reconocer el trabajo parlamentario dentro y fuera de la ponencia es justo reconocer el trabajo

la votación de hoy desde la incredulidad de algunos muestra la posibilidad y el valor de llegar a acuerdos entre diferentes muestra

y el hacer números sin hablar con los grupos parlamentarios antes

y que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que responde a lo que la plataforma nos planteaba y que responde a lo que entendemos que es mejor para la sociedad vasca

se planteó tres condiciones para poder apoyar esta ilp una que el texto a aprobar fuera legal otra que hubiera un respeto a las competencias de la comunidad autónoma y otra que el texto garantizara la seguridad jurídica medioambiental y también de para los ciudadanos vascos hoy tenemos una ley segura para el medio ambiente una ley segura jurídicamente y una ley lejos de buenas intenciones porque desde el comienzo

con una vigencia de veinticuatro horas sabíamos que la prohibición genérica del fracking

conocíamos lo que cataluña aprobó desde su ley del suelo y entendíamos que la vía catalana era la vía que nos podía llevar a proteger el medio ambiente vasco alejarlo del fracking y desde luego que no fuera tumbado por el constitucional al día siguiente

nos marcamos unas líneas rojas y trabajamos en la posibilidad del acuerdo y el de hoy es el resultado del esfuerzo de todos

esta no es la ley que probablemente el grupo parlamentario socialista hubiera presentado pero es la mejor ley que hemos sido capaces de acordar entre el grupo de eh bildu el grupo parlamentario popular

enmiendas de todos los grupos hemos votado en consecuencia hemos votado en contra de

no ha sido fácil pero hoy hemos aprobado una ley que es la primera ley en españa específica que legisla la política del fracking

protección medioambiental jurídica y sanitaria hemos aprobado una ley que garantiza la protección del medio ambiente y hemos aprobado una ley clara concreta y con objetivos alejada

a medio y corto plazo y esta ley es una ley que viene de la mano de la plataforma que nos la trajo al parlamento con ciento tres mil firmas de ciudadanos vascos pero hoy es la ley de la comunidad autónoma vasca

creo que debemos felicitarnos por ello y creo que además podemos hacerlo hoy euskadi está más cerca de sus ciudadanos y está más lejos de intereses de parte hoy euskadi se aleja del fracking lo que esperemos que este gobierno cumpla la ley como no puede ser de otra manera

es una ilp que partió de cuentas matemáticas creyendo que íbamos a llegar al final de una manera determinada es verdad que

igual era un poco pronto pero podía haberse aprobado antes intentar manejar los tiempos a través de ampliaciones de plazo cuando no era necesario nos ha llevado creo a perder algunos meses cuando esto ya podía estar avanzado y es justo decir que

que unos hemos hecho más que otros las elecciones de mayo marcaron un momento concreto el quince de mayo se presentó una moratoria que era absolutamente electoral

los resultados son los que son y entre grupos políticos muy diferentes hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y al final es verdad que

al menos abstenerse por no ser capaces de votar en contra nada más muchas gracias

una historia de lucha por fin hoy cuatro años después de que llegara a este parlamento la ilp vamos a aprobar la ley vasca de custodia compartida es un día histórico para miles de padres y de madres vascos que llevan años luchando para que un momento como este pudiera hacerse finalmente realidad ese momento

y ha llegado gracias a tantos ciudadanos anónimos que han venido trabajando durante tantos años para que fuera posible realidad una ley vasca en este caso de custodia compartida y ha llegado gracias a la labor extraordinaria de asociaciones como kidetza la terraza o iqual que tanto han peleado durante tanto tiempo

la custodia compartida y ha llegado porque llegó a este parlamento vasco una ilp firmada

con frío lluvia y nieve estuvieron durante meses de invierno informando a los ciudadanos y recogiendo firmas

de todo el país vasco hubo incluso algunos valientes que se animaron a llevar a cabo alguna huelga de hambre gracias de verdad a todos ellos

con todos aquellos y aquellas que llevan tiempo sufriendo la ausencia de una ley

y sufriendo por ello situaciones terriblemente injustas con las que esperamos definitivamente acabar gracias a esta ley no podemos mirar a otro lado cuando ha habido tantos ciudadanos que durante los últimos años han sufrido tanto por no tener una ley de custodia compartida

y en concreto estamos defendiendo el derecho de los menores a relacionarse en igualdad de condiciones con ambos progenitores después del divorcio y la separación y estamos defendiendo también el derecho del padre de la madre a cuidar

de la pareja se trata de defender los derechos de los menores y protegerlos en los conflictos de las parejas la custodia compartida es aquella situación legal que establece que en caso de ruptura de la convivencia ambos progenitores se

con respecto a sus hijos menores estableciéndose un régimen de convivencia que les permita relacionarse con ellos por periodos de tiempo igualitarios en la medida de lo posible de forma racional

el interés superior del menor su reivindicación su defensa consideramos que es de puro sentido común y de justicia nosotros más allá de que apoyemos esta ley tal como finalmente ha quedado incluyendo la transaccional que hemos hace algunos minutos el grupo popular el grupo nacionalistas vascos y un servidor mantenemos algunas enmiendas vivas entre ellas la ciento noventa y seis disposición adicional primera en la que dice lo siguiente en el plazo de seis meses de la publicación de esta ley

de información y orientación sobre la mediación familiar y los programas y servicio de orientación

en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley el departamento competente del gobierno vasco diseñará y pondrá en marcha un programa de ampliación del número de juzgados de familia y de equipos psicosociales en euskadi por parte de upyd

de los equipos psicosociales para garantizar que el ejercicio de sus funciones disponga de las suficientes garantías y se ejerza bajo criterios de estricta profesionalidad

de estos aunque las enmiendas que habíamos planteado en este sentido no han podido ser finalmente incorporadas al texto en fin nos comprometemos a seguir trabajando por una regulación adecuada de los equipos psicosociales la enmienda doscientos disposición adicional cuarta en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley el departamento competente del gobierno

de los servicios de mediación familiar en euskadi la doscientos uno disposición adicional quinta en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se pondrá en marcha en el país vasco un fondo de garantía social para situaciones de impago de pensiones alimenticias este era una aportación realizada por los proponentes y aunque no ha sido aceptada consideramos que tiene gran importancia ya que es una enmienda destinada como espíritu de toda la ley a proteger al menor

en cualquier caso en todo caso y al margen de estas enmiendas que no han sido aceptadas nos sentimos satisfechos porque a partir de la aprobación de esta ley la custodia compartida

de la ley además esta ley resuelve bastante bien todos los asuntos relacionados con la cuestión desde la pensión de alimentos cargas familiares

entre otros quizás podría haberse avanzado algo más pero lo cierto es que hemos podido llegar al acuerdo que hemos podido llegar y hemos contado evidentemente con la

y del grupo nacionalistas vascos a los que agradezco muy sinceramente el trabajo realizado en esta ponencia en todo caso se aprueba que la custodia compartida será

necesitará justificación expresa es de justicia y lo mejor para todos y por qué digo que es de justicia y que es lo mejor para todos

a la vista de las cosas que han ocurrido en los últimos años que la custodia compartida respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres elimina las dinámicas de ganadores y perdedores

y la colaboración en los aspectos afectivos educativos y económicos es el sistema que mejor respetaría el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo

y de modo regular y puede servir para evitar sentimientos negativos de los menores como el sentimiento de culpa es el sistema que mejor garantizaría y garantizará una verdadera igualdad de derechos oportunidades y de trato

educar disfrutar y responsabilizarse en todos los órdenes de sus hijos e hijas

como pareja es el sistema que mejor evitaría situaciones claramente injustas y de desigualdad

en los últimos tiempos por cierto como decía al principio no veré esas situaciones injustas o verlas y no tratar de evitarlas es a nuestro entender absolutamente imperdonable y porque digan lo que digan los manipuladores del lenguaje la custodia compartida es una medida

en la buena dirección la necesidad de impulsar la custodia compartida y de defender la custodia compartida de los menores en los procesos de separación

por diversas instituciones el ararteko pero también distintas asambleas legislativas españolas diputaciones provinciales

y el propio senado español también en su momento hoy por lo tanto aprobamos la ley vasca de custodia compartida en el parlamento vasco es por ello un día

la batalla debe continuar y seguimos en la lucha desde upyd más pronto que tarde lograremos una ley nacional de custodia compartida

ese momento todavía no ha llegado estamos todavía a mitad de camino hemos conseguido que haya una ley vasca de custodia compartida por eso digo que seguimos en la lucha hasta conseguir que haya también una ley nacional de custodia compartida que haga justicia a tantos ciudadanos anónimos que durante tantos años han sufrido tanto muchas gracias

mesedez mesedez por favor os pido silencio habrá momento para el aplauso pero

zela hoy es un día importante porque se aprueba una ley ampliamente demandada por asociaciones colectivos

quiero dar las gracias en primer lugar al proponente de la iniciativa a kidetza y también al resto de las asociaciones que también estáis hoy aquí presentes

el objetivo de esta ley agradecer también el esfuerzo que se ha realizado en la recogida de firmas de esta iniciativa legislativa popular

a todos de que era una problemática pendiente y una asignatura pendiente quería agradecer también a todos los grupos

y hacemos posible que salga adelante pero también a los demás porque creo que si ha habido un objetivo común entre todos los grupos con representación

de las posiciones de cada uno de ellos ha sido el objetivo compartido de elaborar la mejor ley posible la custodia compartida

que más se adecua a la realidad social hay que señalar en este sentido que la bis normativa se ha visto claramente superada

como todos sabemos la custodia compartida con la necesidad de que hubiera por un lado un acuerdo entre las dos partes

y el informe preceptivo del ministerio fiscal esta regulación

en algo absolutamente excepcional y la propia doctrina jurisprudencial ha ido corrigiendo esta regulación obsoleta

y de las necesidades de la sociedad y señorías los representantes políticos estamos precisamente para dar respuesta

necesidades problemas y demandas que se plantean en la sociedad una de ellas esta me parece muy importante comentar hoy aquí la redacción del artículo ocho de esta ley en donde se elimina ya por fin la posibilidad de veto a la custodia compartida

en interés de los hijos que la guarda y custodia de los hijos e hijas menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida o por uno solo de ellos

no será obstáculo ni motivo suficiente para no otorgar la custodia compartida en interés del menor y el juez a petición de parte

y atendiendo a una serie de circunstancias como se puede apreciar también esta ley es absolutamente garantista y toda ella pivota en salvaguardar el interés del menor como no podía ser de otra manera

la jurisprudencia también ha establecido que el sistema de custodia compartida debe considerarse algo normal

opción posible para nosotros desde luego y siempre lo hemos tenido claro y lo hemos dejado claro en todos los pronunciamientos en los que se ha debatido esta cuestión y hoy lo quiero hacer también

conjugar los derechos por una parte los derechos de los hijos a tener relación equilibrada con ambos progenitores una relación equilibrada continuada

y también con su familia extensa porque también hay que tener en cuenta

y el derecho y el deber de los padres en la crianza y educación de los hijos su igual corresponsabilidad y obligación para con los hijos todo ello

los padres y las madres siguen siendo padres y madres y también independientemente de la relación que tengan ellos por lo tanto para nosotros es la opción que más avanza en la conciliación en la famosa conciliación y en la corresponsabilidad va a permitir hacer efectivo el derecho a la igualdad

y va a permitir también situar al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad en los procesos de separación divorcio o ruptura de la convivencia ahora va haber realmente una situación de igualdad en el mismo plano de los hombres y las mujeres

directa de los dos progenitores y sus familias con los hijos con las familias extensas que también como decía hay que nombrarlas y tenerlas muy en cuenta

en el sentido también de que no sean utilizados como moneda de cambio en todos estos procesos que lamentablemente también hay mucho de eso quiero señalar también el aspecto de la vivienda que me parece importante como queda regulado en defecto de acuerdo será la que sea más conveniente para salvaguardar el interés superior de los hijos preferentemente al progenitor a quien corresponda la guarda y custodia si es la mejor opción como decía en interés de los hijos pero también

a aquel progenitor que no tuviera la custodia la guarda y custodia

mayores necesidades de acceso a la vivienda y ello es compatible con el interés del menor creo que en esta previsión también se hace justicia y se atienden las necesidades y demandas sociales planteadas en este ámbito hemos mantenido dos enmiendas quiero también yo decir que hemos llegado a una transacción en el tema de la

y en ese sentido se podrán revisar los convenios reguladores y las medidas judiciales

y el juez estime que se dan las circunstancias recogidas en la misma como decía habíamos presentado

habíamos presentado más enmiendas pero mantenemos dos enmiendas para este pleno

de protección oficial de modo que en las situaciones de ruptura de la convivencia

siempre que haya hijos a su cargo y otra enmienda para que en el plazo

se ponga en marcha un fondo de garantía para situaciones de impago de pensiones alimenticias

a lo largo de estos años ha defendido el grupo popular también a través de numerosas propuestas

en definitiva y acabo por no extenderme más creo que es un día importante y creo que hoy damos respuesta a una necesidad que se ha planteado damos respuesta a atender la custodia compartida haciéndonos eco de esa demanda social

creo que hoy es un día importante porque al final creo que vamos a hacer la vida más fácil

y creo que los que somos representantes políticos tenemos que estar para eso desde luego sin ninguna duda besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

gracias presidenta buenos días señorías buenos días a todos los representantes de asociaciones y ciudadanos que han venido a compartir con nosotros el debate de esta ley bien

como decía señorías el parlamento vasco va a aprobar hoy una mala ley gallastegui andrea momentu bat mesedez eskatzen dizuet
os pido por favor el que quiera escuchar que escuche y si no que se vaya fuera

una ley que ha mejorado señorías a lo largo de la tramitación parlamentaria gracias

a las aportaciones del grupo socialista pero que no es suficiente para que pueda lograr y décimos que es mala por varias razones entre otras por incongruente por innecesaria por ineficaz para el objeto que pretende y lo que es peor porque va a producir más problemas que soluciones y me voy a explicar incongruente por ejemplo dedica más desarrollo legislativo a cómo se adjudica se atribuye o se dispone de la vivienda familiar u otras viviendas familiares entre comillo esto de viviendas familiares otras entre los progenitores que a la propia regulación

de los niños innecesaria porque impunidad no supera ni el código civil ni la jurisprudencia del tribunal supremo ni la aplicación

que ha desterrado la excepcionalidad prevista

para el objetivo pretendido porque a pesar de lo que se recoge en la exposición de motivos el artículo nueve señor maneiro no consagra el sistema de custodia compartida ni como preferente

sino como una alternativa más y esto frustra el elemento nuclear de la proposición inicial

que soluciones y me explico voy a poner unos ejemplos ilustrativos qué se entiende por otras viviendas de uso familiar vamos a adjudicar el uso por ejemplo de la casa del pueblo

con sus padres hermanos sobrinos primos etcétera

podrá determinar un derecho de relación con los menores primos amigos nuevas parejas familiares de las nuevas parejas de qué hablamos cuando décimos que el juez obligará a una sesión informativa sobre mediación subrayo obligará y entrecomillo sesión informativa sobre mediación

es en esencia voluntaria sino será otra cosa pero mediación qué significa que se podrán revisar convenios o medidas judiciales establecidas en sentencia anterior a la entrada en vigor de la ley si no han cambiado las circunstancias

si no ha cambiado la situación de los progenitores ese es el meollo de la cuestión para provocar una modificación de las medidas o si por ejemplo en el convenio o medidas

no solicitó la custodia compartida en fin podíamos seguir así

garantiza la mayor protección de los intereses de los menores que además de nuestros hijos siempre han sido el bien jurídico a proteger

ejercicio responsable de la paternidad y afirmamos también rotundamente

en los procedimientos de separación o divorcio o de ruptura de la convivencia sino que sobre todo además de un derecho es un deber una obligación que tenemos

relación convivencial sea del tipo que sea desde el mismo momento del nacimiento de nuestros hijos así

aún cuando la evolución es positiva no se da y eso no es otra cosa que el ejercicio de la responsabilidad

señorías cuando se aprobó la ley de divorcio grupos y sectores sociales representados en esta cámara todos tenemos memoria

no creían en el divorcio lo denostaban incluso abjuraban de ello sin embargo nosotros los socialistas sosteníamos entonces

y obligaciones al ámbito de lo más privado al ámbito de esos proyectos vitales de convivencia a los que cuajan y perduran y también a los que se malogran

o de unión y esta ley nuestra ley de divorcio que supera con nota

se ha ido adaptando señorías a las demandas producidas por la evolución de nuestra sociedad casi al mismo ritmo de los cambios y por eso nosotros los socialistas introdujimos el sistema de custodia compartida en nuestro ordenamiento jurídico con la reforma del código civil

y esta ley actualmente en vigor permite la opción de la adopción del sistema de custodia compartida no solo de común acuerdo sino también a petición

por tanto la ampliación de derechos desbrozar caminos hacia la igualdad garantizar la protección integral de nuestros menores solidaridad equidad y demás valores superiores

todo que ver con los gobiernos socialistas en este país eso es lo que esencialmente defendemos abundando la custodia compartida sin acuerdo

sino porque lo han ratificado todos y cada uno de los comparecientes que han pasado por este parlamento en el proceso de elaboración de la ley voy a recordar empezando

viceconsejería de justicia del gobierno vasco emakunde y sobre todo

por cierto firme defensora de la custodia preferente que manifestó con absoluta rotundidad

casi de oficio así que negar la evidencia es cuando menos absurdo ahora bien que nadie piense que se pueden otorgar

porque nuestro país rige el principio de justicia rogada en el proceso civil recogido en el artículo doscientos dieciséis de la ley de enjuiciamiento civil conforme al cual los tribunales civiles deben decidir

los asuntos objeto de enjuiciamiento en virtud de las aportaciones de hechos de las pruebas y de las pretensiones de las partes así que vamos a dejar claras algunas cosas mienten rotundamente quienes afirman con absoluta

que los socialistas estamos en contra de la custodia compartida eso es obvio se equivocan a nuestro juicio quienes afirman que la custodia compartida

la igualdad es lo que traerá más custodias compartidas bien sea de común acuerdo o sin él que de todo

sin duda para nosotros los socialistas la solución está en primer lugar en concitar

y entendimiento entre progenitores para asumir que el acuerdo y el consenso es necesario para cuidar compartidamente a nuestros hijos y que todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar en relación

a su desarrollo vital las hemos de tomar preferiblemente de manera conjunta y que esto es así no solo porque lo dice el código civil

sino porque hay una cosa que todo el mundo conocemos y que se llama sentido común así que si eso no se produce hay que hacer un traje a medida un traje que abrigue los derechos de nuestros niños y garantice

desarrollo integral y eso señorías ocurrirá y sucederá a veces con una guarda compartida o con una guarda monoparental

madre madre en fin no de padre y madre necesariamente

no es solamente un derecho de los padres ni una herramienta para resolver problemas de índole ni económico ni de gestión patrimonial repetir hasta el aburrimiento

ni en lo que nosotros la sociedad necesitamos y aunque haya personas que con buena fe puedan caer en esa

el devenir de los acontecimientos señor maneiro siempre ha demostrado que la imposición de un sistema

ni la igualdad ni las bondades de lo que no es esencialmente bueno y esta no es una buena ley no es una buena ley y por eso vamos a emitir nuestro voto ni en un sentido global en el que luego explicaremos

pero la razón principal de nuestro voto en ese sentido

la participación activa de la ciudadanía en la elaboración de su propio marco de convivencia y de regulación de sus relaciones privadas apostamos por la igualdad que es uno de los principios en los que se fundamenta nuestra acción política y eso nadie puede dudarlo ni negarlo

de las personas en este país lo avala voy terminando presidenta creemos en el cuidado compartido de nuestros hijos

y mientras tanto nuestro deber como legisladores es garantizar el interés superior de los menores en esos procesos

con soluciones individualizadas que permitan la opción de la modalidad

para nuestros niños esa es nuestra posición esta ley
no logra el objetivo de mejorar y garantizar la situación de nuestros hijos nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea

de este proyecto de ley han eliminado la mayor parte de estas cuestiones cuestiones tan graves que pasaban por

la liquidación automática de la vivienda con lo que eso supone para dejar a las y los menores sin un techo

de las y los menores no ser suficiente una denuncia por violencia machista para considerar que esta custodia no fuera la idónea

punto hacer referencia a las cifras de la consejera de seguridad de dos mil catorce seis mil expedientes abiertos por denuncia machista un solo expediente

el texto que hoy sometemos a votación no podemos aprobarlo si bien se ha mejorado no podemos aprobarlo porque sigue anteponiendo el interés

superior del menor es contradictorio en sí mismo hablar del interés superior de las y los menores y querer instaurar un único modelo de guarda y custodia emakunde el fiscal superior de justicia del país vasco la viceconsejera de justicia

en esta cámara lo han dejado claro no existe una solución única esto no lo dice eh bildu esto lo dice muchísima gente por tanto es demagógico

abogamos por soluciones individualizadas por ese traje a medida que nos dará la mejor solución para cada

en interés superior de las y los menores otra cuestión que se ha puesto de manifiesto en esta cámara es la obligatoriedad del servicio de mediación algo que contraviene en sí mismo la no lo décimos nosotras lo han dicho múltiples juristas

no tiene ningún sentido y sobre todo en casos de violencia machista que recordemos que solo se denuncia un quince por ciento de estos casos va a ser completamente perjudicial

si verdaderamente queremos primar ese interés superior de las y las menores por tanto tenemos que llevar a cabo exhaustivo el juez tendrá que llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada caso de qué es lo mejor para el interés superior de las y los menores hasta este momento se ha querido poner de manifiesto que esta ley es una política

y en ese sentido es necesario aclarar que esta ley no es ninguna política de igualdad y no lo décimos solo nosotras señorías lo dice emakunde el órgano sí encargado de las políticas de igualdad en esta comunidad autónoma que afirma que ante quienes argumentan que la custodia compartida promoverá la igualdad hay que decir que

de guarda y custodia vendrá precisamente por un profundo cambio social en el que la corresponsabilidad en el que el cuidado compartido desde el nacimiento de las niñas y los niños sea realidad sorprende que quienes llevan a cabo este tipo de iniciativas en favor de una supuesta corresponsabilidad no hayan llevado a cabo iniciativas que vayan en pro de permisos de paternidad

excedencias etcétera iniciativas que habríamos apoyado porque esas son iniciativas que sirven para avanzar en ese camino la igualdad por tanto para nosotras es fundamental hablar de corresponsabilidad

es fundamental trabajar para construir ese escenario en el que la división sexual del trabajo no sea una realidad como es hoy en día y en el que los cuidados no recaigan sobre todo en las mujeres trabajar por un escenario en el que el cuidado compartido y la corresponsabilidad sean lo que nos unen y lo que nos sirve para avanzar hemos presentado treinta y tres enmiendas a esta proposición

y progenitores a los intereses de las menores ya se ha dicho aquí no era necesario llevar adelante una ley la propia legislación actual establece la posibilidad

parental se van dando a cabo de manera natural estas custodias compartidas en dos mil ocho teníamos un siete por ciento

un doce por ciento por tanto no era necesario una legislación actual

ni a favor ni en contra de la custodia compartida estamos a favor del interés superior del menor y en ese caso la guarda y custodia ideal es la que se adecúa a cada tipología de familia y es muy importante dejar aquí de manifiesto y no solo lo décimos nosotras emakunde un órgano que ha sido completamente ninguneado por el grupo que sustenta el gobierno ha sido completamente ninguneado el órgano que lidera las políticas de igualdad en esta comunidad

diciendo que si bien ha habido cambios en el texto porque era muy grave lo que proponía kidetza sigue sin anteponer el interés superior de las

al órgano encargado y que lidera las políticas de igualdad en esta comunidad

divorcio o ruptura de la convivencia de sus progenitores y velar porque continúen teniendo una relación lo más directa y constante posible

familias y a día de hoy el sistema que creemos

es el de custodia compartida queremos detenernos a continuación en los aspectos más destacados de la ley en aquellos que nos parecen más novedosos

otros portavoces el juez a petición

adoptará es imperativo la custodia compartida siempre que no sea perjudicial para el interés de los y las menores y atendiendo

a hasta la j que después explicaremos por lo tanto deberá ser solicitada pero a diferencia de la legislación en vigor y este matiz es muy importante no permitirá el derecho de veto de uno de los progenitores esto es hasta ahora

y el otro se negaba era muy difícil obtenerla y todo ello a pesar de que

incluso se han pronunciado sobre la no necesidad de llevarse bien los progenitores para poderla

también han dejado establecido y es postura consolidada que si alguien no quiere la custodia compartida no tiene sentido otorgársela por eso rige el principio de petición de parte de justicia rogada asimismo menciona el artículo

si es perjudicial para los menores en concordancia por velar siempre

que está en la voluntad de los legisladores en todo el articulado de esta ley

el juez habrá de tener en cuenta una serie de circunstancias que quedan recogidas

h del mismo artículo siguiendo también

y entre estas circunstancias expresamente se recogen entre otras la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores y su vinculación afectiva el número de hijos e hijas así como sus edades opinión de los y las menores cuando tengan suficiente juicio para poderla manifestar cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes respecto a los hijos e hijas

actitud de garantizar la relación de los hijos e hijas con ambos progenitores y sus familiar arraigo social

posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar de cada progenitor ubicación de sus residencias habituales así como apoyos con los que cuenten como se ve una serie de requisitos que ayudarán al juez a tomar la decisión final pero que insistimos que hablan de que

es un imperativo siempre y cuando los requisitos y la situación concreta así y que sea siempre en beneficio de los menores por lo tanto la ley insistimos pone a disposición del juzgador los requisitos a examinar para velando siempre

compartida y que deje de ser excepcional insistimos examinados todos

si lo estima pertinente para el caso concreto aunque la otra parte se niegue

además del interés superior de los menores se podrán tener en cuenta criterios de necesidad de los progenitores y titularidad de la vivienda y todo ello

uno de los aspectos más conflictivos en los casos de ruptura como es el caso de la vivienda y siempre insistimos en que quede garantizado el bienestar de los hijos e hijas que deben contar con un lugar digno para vivir lo habitual será que la vivienda se adjudique a la persona que tenga

pero podrá otorgarse al progenitor no custodio cuando se den una serie de requisitos establecidos en la propia ley como puede ser la existencia de otra vivienda ingresos

el bienestar de los y las menores respecto a la disposición transitoria nos parece importante que la ley pueda ser aplicada a las parejas con sentencias

y cuando el juez estime que se dan los requisitos establecidos en el mencionado artículo

solo nos hemos reservado una enmienda de supresión sobre una de las disposiciones adicionales beste guztiak adostu egin ditugu edo erretiratu adostasun

sí muchas gracias presidenta decía la señora gallastegui que gracias a sus aportaciones esta ley ha salido mejorada

han sido cero con lo cual se demuestra que la actitud del grupo socialista no era constructiva

absolutamente imprescindible usted considera que es

nosotros consideramos que es indispensable usted considera y la representante del grupo eh bildu que es una mala ley nosotros pensamos que es una buena ley

ineficaz y nosotros pensamos que va a ser una ley eficaz que va a resolver los problemas de miles de ciudadanos que en los últimos tiempos han sufrido

alejados de la realidad que no atienden a determinados problemas que han padecido

presentes su discurso el discurso en este caso de eh bildu y del grupo socialista suena a viejo suena a antiguo suena a

anclado en el pasado y sobre todo superado por los acontecimientos y alejado absolutamente de la realidad viven en este caso ustedes alejados de la realidad según ustedes no hay que escuchar a la sociedad vasca

no hay que escuchar a esas asociaciones que han trabajado durante largos años para intentar hacer una ley absolutamente indispensable según ustedes hay que escuchar

juristas que han pasado por la comisión correspondiente del parlamento esos sí conocen la realidad los padres y las madres que han sufrido durante largos años la ausencia de una ley de custodia compartida según ustedes y según la señora gallastegui son

pero que utilizan argumentos falaces no sé si como consecuencia de su maldad supongo que en mi caso será maldad y en el caso de las personas que han asistido en este pleno

despiste nosotros al parecer según la señora gallastegui y la señora urrea

y que no sabemos atender a la realidad social hay que escuchar a esos eminentes juristas que han venido a la comisión a tratar de vendernos

o de la contraria pues no nosotros damos respuesta a miles de ciudadanos vascos que llevan reclamando una ley que es absolutamente justa y de justicia y es una ley digan ustedes lo que quieran una ley profundamente

insistiendo constantemente en los últimos tiempos en las bondades del artículo noventa y dos del código civil que introduce por primera vez la custodia compartida en españa aunque por cierto cada vez con menos vehemencia y cada vez con menos credibilidad ese artículo es claramente insuficiente porque únicamente plantea la custodia compartida de manera

el derecho de veto y por lo tanto esta ley supera claramente esto y lo que instaura claramente en nuestra opinión es la custodia compartida

la juez tendrá que justificar en su caso cuando no otorgue la custodia compartida por eso consideramos que se instaura la custodia compartida

general y siempre en beneficio del menor ese ha sido nuestro objetivo

del menor ustedes hablan permanentemente de la corresponsabilidad están ustedes acusando a miles de padres y de madres que han sido injustamente tratados

o madres están ustedes diciendo eso porque ese argumento me parece lamentable y es absolutamente falso ha habido miles de padres y de madres que se han comportado

hijas por lo tanto dejen de utilizar ustedes ese argumento porque es absolutamente falso ha habido situaciones claramente injustas

mucho durante los últimos tiempos a pesar de haber sido perfectos padres

perfectamente bien lo que había era en fin un discurso antiguo antiquísimo que va a ser superado y está siendo superado por los acontecimientos esta ley es claramente progresista y efectivamente instaura la custodia compartida

general en fin lo mantengo como lo he dicho al principio la custodia compartida es la mejor opción para los menores y por eso la defendemos digan lo que digan esta es una ley absolutamente indispensable y profundamente

que hoy se hace justicia y que se resuelve una cuestión pendiente y desde luego se nos hace difícil de entender como seguramente a muchos ciudadanos

y que luego ponen trabas a la hora de la verdad cuando estamos buscando soluciones a una cuestión esencial

y que además es una cuestión que avanza claramente en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y avanza en la corresponsabilidad y en la conciliación creo que no hay nada más progresista que estar

poner mecanismos legales encima de la mesa corrigen injusticias avanzan en una mayor equidad en una igualdad y sobre todo en esa corresponsabilidad y conciliación de la que a todos se nos llena mucho la boca por lo tanto hechos y no palabras y creo que hoy

creemos en las políticas de conciliación en la corresponsabilidad y en avanzar de forma efectiva en la igualdad

hoy damos un paso importante creo también despejar muchos miedos que siguen teniendo formaciones

cuando claramente porque además los padres y las madres que están en estos procesos

son los primeros interesados en salvaguardar el interés de los hijos es que cómo vamos a poner sospechas

en salvaguardar ese interés de los hijos lo plasmamos en la ley

ellos mismos van a ser los primeros que quieren lo mejor para sus hijos y cuando lo mejor para sus hijos sea la custodia compartida esa custodia compartida

en cuenta y no haber posibilidad de veto como pasaba con la regulación hasta ahora en que la solicitud de custodia compartida cuando se solicitaba se daba o no

absolutamente excepcional porque si alguien no quería no se daba otra cosa es que la doctrina jurisprudencial ha ido corrigiendo esa regulación actual del código civil porque obviamente las leyes y los jueces como operadores jurídicos cuando aplican las leyes se tienen que adaptar a esa realidad que

que la regulación actual no servía y era obsoleta por lo tanto yo pido

de estereotipos aquí somos personas y no se puede decir ni que uno son peores padres otros mejores madres aquí estamos hablando

pero que no les tiene por qué eso afectar a la relación que tienen con sus hijos porque ellos y sus familias extensas también quieren seguir teniendo los dos los dos porque tienen derechos a ello y también los deberes correspondientes a seguir teniendo

yo creo que eso es algo de sentido común y algo que desde luego va absolutamente en correlación con los tiempos que vivimos y lo demás y es mirar al pasado y desde luego yo lamento que haya partidos hoy aquí que encima coinciden con fuerzas de izquierdas que desde luego sigan mirando para atrás cuando la sociedad especialmente también los colectivos que vuelvo a agradecer su esfuerzo

nos han dicho que hay que tirar para adelante voy acabando señora presidenta el mundo avanza y desde luego los que tenemos una responsabilidad políticas no podemos ser ajenos a que el mundo avanza

va en una dirección y desde luego consideramos que esta ley es absolutamente necesaria

y para nosotros al margen de estereotipos y de sexos estamos hablando de personas vamos a hacer la vida más fácil a muchos padres a muchas madres a sus hijos que no tienen la culpa de nada y a las familias extensas abuelos tíos

con esos niños y por lo tanto vamos a resolver muchos problemas

que nos está oyendo que nos está siguiendo hoy le vamos a dar una oportunidad

y desde luego que resuelva sus problemas y creo que nuestro deber

a los ciudadanos siempre que sea posible y aquí era posible y por lo tanto desde el grupo popular adaptamos ese compromiso desde el principio eskerrik asko garrido andrea

de intervenir en este segundo grupo fundamentalmente porque creo que las posiciones del grupo socialista y cuál es el planteamiento que nosotros hemos hecho a lo largo de todo el tiempo de la tramitación de la ley es el que es y esta muy muy muy muy claro voy a repetir otra vez que de lo que se trata fundamentalmente

laura garrido ni establecer ningún tipo de derecho de veto del que habla por ejemplo la señora arregi o el señor maneiro

decir que en las relaciones paternofiliares cuando se rompe un matrimonio o

se establece un derecho de veto es decir algo que no es rigurosamente cierto es cierto que en ocasiones se ha podido dar eso de la misma manera que se puede hablar de situaciones como por ejemplo

en cualquier caso de lo que se trata fundamentalmente es que cuando haya acuerdo entre progenitores

y cuando no hay cada uno de los progenitores lleva su planteamiento que se le puede llamar convenio regulador se le puede llamar medidas se le puede llamar lo que sea eso se hace ahora

en función de todos esos principios de justicia rogada que además tienen mucho que ver con lo que uno suplica en la demanda al final y eso es una cuestión de valoración de pruebas

la responsabilidad que cada uno haya ejercido antes nadie está diciendo nadie ha hablado aquí salvo ustedes de malos padres o buenos padres o padres que son

yo doy por hecho que todos los padres lo son todos los padres todas la madres doy por hecho y cuando hablamos de que se tiene que hacer un traje a medida estoy diciendo que será buena una custodia

que será buena una custodia otorgada en este caso o concedida

y todo eso no solamente nos han dicho todos los comparecientes que han venido por aquí

porque aquí han venido muchas asociaciones que están en contra de la custodia compartida también y entonces de lo que se trata no es de defender lo que uno defienda porque hay una presión de un tipo específico o no

y si hay algo que creo que hemos hecho siempre ha sido manifestar a las asociaciones que estaban a favor de este sistema cuál era nuestra posición sin ningún tipo de dudas y efectivamente no metimos enmiendas no metidos enmiendas por una razón muy sencilla porque nosotros consideramos y de hecho así se considera y lo dice exactamente incluso la más

me refiero en el ejercicio de la profesión de adjudicación de custodias es decir en la judicatura

en este país se estaban dando custodias compartidas casi de oficio y nosotros consideramos que esa ley que tenemos

crea muchos menos problemas que esta ley que han aprobado ustedes pero eso es una apreciación que es absolutamente respetable exactamente igual que yo respeto la que no es mía que es la de ustedes entonces

y es que cuando uno viene aquí a hablar y a dar su opinión

y tiene por detrás probablemente tanto apoyo social como puede tener la suya otra cosa es que cada uno dentro de sus opciones elija la que considera mejor y nosotros consideramos mejor para que quede claro como el agua clara

lo mejor que se puede hacer en cada situación es individualizar la situación y eso no significa

tenga más derechos que otros porque entre otras cosas usted sabe muy bien si es que conoce de lo que estamos hablando sabrá muy bien que en estos momentos hay custodias exclusivas que

en puridad a la hora de ejercerlas son custodias compartidas porque no hay ni un solo juzgado en este país que no otorgue visitas extensas visitas que por cierto es un término que no me gusta

los niños los fines de semana y tres días a la semana no están bajo su custodia o están bajo la custodia de quién vamos a ser serios señor maneiro porque a mí me parece que cualquier ley que mejore la situación que vaya a garantizar los derechos de los menores siempre será buena

esta ley no va a cambiar sustancialmente nada en muchas cosas pero sí va a traer problemas en otras y eso es ratifico íntegramente todos

a favor de la guarda y custodia compartida quién no podría haber firmado porque automáticamente se nos viene a la cabeza esa corresponsabilidad ese cuidado

lo que no sabía el conjunto de esta ciudadanía que ha firmado es la posterior iniciativa que se ha traído a este parlamento iniciativa que

por qué eliminaron la mayor parte de propuestas que se veía claramente que anteponían los intereses de las progenitoras y progenitores a los intereses

contradiciendo y ninguneando lo que vuelvo a repetir dice y afirma y sigue manteniendo nada más y nada menos que la responsable de las políticas de igualdad señor urkullu de esta comunidad ninguneado absolutamente y eso es absolutamente vergonzoso y hay que poner de manifiesto que no solo es una postura que hemos mantenido no solo hemos hablado

de la importancia de anteponer los intereses de las y los menores a los intereses de las progenitoras y progenitores sino que se ha hablado aquí de la importancia de no establecer un tipo específico de guarda y custodia

cada menor cada progenitor es un mundo

escucha significa diálogo significa entendimiento y esto en muchas familias puede no darse por tanto el juez es quien tiene que definir en cada caso qué es aquello que va a suponer ese bien superior de los y las menores en reiteradas ocasiones hemos tenido que escuchar

del niño y es que se dice se reivindica el cuidado de los niños y las niñas el cuidado compartido ese derecho que tienen a ese cuidado compartido

posterior a una ruptura tienen derecho desde el momento del nacimiento señorías es que aquí parece que estamos en una situación en la que hemos alcanzado la igualdad

queda mucho por hacer a medida que avanzamos en igualdad a medida que los padres van corresponsabilizándose del cuidado de las hijas e hijos se va

de una manera corresponsable en caso de una ruptura por muy difícil que esta sea va anteponer los intereses de los

menos demagogia en esta cámara esta ley lo que pretende aprobar

nosotras que quede muy claro no estamos ni a favor ni en contra de la custodia compartida estamos a favor

obligadas a subordinarse a un tipo de guarda y custodia sin anteponer una serie de circunstancias muy importantes y hacía referencia al artículo ocho punto tres que establece

señorías para que esta ley tuviera en cuenta ese interés verdaderamente tendría que establecerse que el juez a petición de parte otorgará la guarda y custodia que mejor se adecue a los intereses y esas menores atendiendo a una serie de requisitos no solo eso sino que además el artículo ocho punto dos establece que las malas relaciones entre ambos o incluso la negación de una de las partes no será obstáculo para no otorgar una custodia compartida eso es poner el interés superior del menor por encima

a nuestro juicio la ley que vamos a aprobar va a ser una buena ley seguramente no será perfecta porque la perfección es casi imposible y seguramente si hubieran estado otras personas en la ponencia quizás

pero hemos trabajado todas las personas que hemos formado parte de la ponencia

la señora gallastegui que no ha presentado enmiendas ha participado en alguna de las reuniones de la ponencia

su parecer al respecto creo que entre todos y todas hemos conseguido mejorar el texto y vamos a tener por fin una ley de custodia compartida en euskadi y esta ley que a nuestro juicio viene avalada por esas ochenta y cinco mil firmas si que recoge

el sentir de la calle el que muchas personas no se sentían a día de hoy amparadas por la legislación

y por eso creemos que era necesaria esta ley porque desde luego las interpretaciones de los tribunales bienvenidas sean han mejorado han flexibilizado

pero no dejan de ser interpretaciones judiciales que modificado en cualquier caso los miembros de ese tribunal modificarse también su sentir por lo tanto nos parece importante respecto a la violencia machista que utilizaba la señora urrea en su primera intervención es evidente

que si existen meros indicios habla de indicios no habla de sentencias no habla de que no se otorgará la custodia compartida

es una ley y la ley ha de ser genérica tiene que regular

que serán los que el juez al que le toque conocer el caso concreto de esa separación esa ruptura habrá de valorar para siempre que estime en beneficio del menor para que pueda otorgar la custodia compartida y no exista

con la legislación actual ese derecho de veto existía en la práctica y se llevaba a la práctica en demasiadas ocasiones a nuestro juicio el tema de individualizar caso por caso traje a medida etcétera para eso se han establecido los requisitos en la ley y para eso también además el propio tribunal supremo los ha ido matizando y los que se han recogido en la ley son los que los propios tribunales están barajando tampoco es que se nos hayan ocurrido a los miembros de la ponencia

establecido esos requisitos son los que ya vienen aplicando los tribunales

a medida a nuestro juicio una vez que se produce la ruptura la separación de los progenitores los hijos tienen derecho a estar el máximo tiempo posible tanto con su padre como con su madre exactamente igual

antes de la ruptura y explíqueme señora gallastegui cómo se consigue esto si no es a través de una custodia compartida que tampoco décimos que tenga que ser cincuenta cincuenta

esos niños y niñas mejores tienen derecho a tener una relación

del máximo tiempo posible y evidentemente la máxima calidad posible tanto con su padre como con su madre producida la ruptura nosotros no vemos

otro tipo de custodia mejor que el de la compartida para que lo pueda asegurar o garantizar y señora urrea no le voy a permitir decir que hemos ninguneado

a ninguna persona de todas las que han venido ni mucho menos a emakunde otra cosa es que no compartamos cien por ciento lo que dice emakunde como usted tampoco ni su grupo comparten muchas de las cosas que dice emakunde

en varias de las comparecencias lo hemos seguido manteniendo en la ponencia a nosotros nos parece terrible el hecho de la violencia de género

pero desde luego el mezclar violencia de género con custodia compartida ya le he dicho que el código civil lo deja meridianamente claro y en esos casos los jueces

pero no compartimos cien por ciento la postura que ha venido manteniendo y al final vamos a aprobar esta ley

y hacer justicia y a mejorar desde luego

primero la transitoria erdibideko zuzenketa

y seis y la doscientos y la ciento noventa y nueve y por otro lado la ciento noventa y siete y doscientos uno barkatu laurogeita hamasei eta

ciento noventa y seis doscientos y por otro lado ciento noventa y siete y doscientos uno pues votamos separadas todas entonces

no el dos aparte no había no había